hutsune nabarmenak dituela proposamenak por otra parte el resto de los grupos han presentado una serie de enmiendas

por lo menos en algunos de los puntos podríamos suscribir perfectamente los puntos sobre la paralización

expediente de regulación de empleo que afecta a toda la plantilla

los trescientos sesenta y cinco días del año con apertura de ventanillas y el mantenimiento del puesto de inspección fronteriza como exigencia para no restar capacidad al aeropuerto por supuesto que suscribimos

ya que entendemos que es desde la gestión propia desde donde se aportará la solución

y se dará coherencia a este modelo de infraestructuras desde una perspectiva de país con los grupos que no podemos compartir nada o casi nada con lo que proponen es con el partido popular y con upyd ya que unen su propuestas tanto al tren de alta velocidad como a espacios temporales

antes de que se llevasen a cabo sus demandas por lo tanto parece que carecen de disposición para la solución del conflicto upyd que acaba de abandonar la sala

un totum revolutum en el que habla del tranvía de gasteiz del problema laboral posiblemente en los términos más claros

de la intermodalidad de gasteiz y solo le falta meter el entramado institucional para que su iniciativa sea lo más completa

y me imagino que cuando ha hablado de llevar ramales a foronda se refiere a que es necesario hacer en foronda una inversión me imagino con dinero público para que entren compañías de viajes que puedan darle algún sentido a esos ramales del tren de alta velocidad llevándolos a foronda porque sino lo que no podemos entender es que siendo un aeropuerto logístico se esté exigiendo una conexión con el tren de alta velocidad que como sabemos bien todos en esta sala no puede simplemente por las amortizaciones que conllevaría llevar a cabo ningún tipo de transporte de mercancías

no solo eso también conocemos que en el caso de foronda el respaldo institucional está siendo más bien escaso más allá de declaraciones huecas y vacías de algunos de sus dirigentes

sobre las estructuras de su partido ni tan siquiera con la presencia en esta cámara que tienen realmente la capacidad para solucionar este problema de hecho

hay otros aeropuertos como ya se han mencionado anteriormente que han estado a punto de correr la misma suerte que foronda pero ha sido la determinación política de las instituciones las que han conseguido

que foronda se había convertido en uno de los aeropuertos de carga más importantes tanto por su localización como por las características medioambientales y geográficas de araba

tanto por las inversiones que se hicieron en el pasado como por la disposición que tiene como centro logístico ya que se encuentra en un lugar idóneo dentro de la nacional uno cercano y accesible a todos los centros industriales y a las plataformas logísticas del territorio de araba

en un año todo esto ha sido eliminado por el estado español y por sus intereses económicos pero también por la relativa dejadez a la que ha sido condenada el aeropuerto de foronda

el partido popular ha priorizado y prioriza al aeropuerto de zaragoza y de burgos

obvios también se esconden motivaciones políticas más obvias todavía más allá de las apuestas estratégicas y prioridades de los otros corredores de mercancías

este no deja de ser un tema político en esencia ya que por un lado tenemos que tomar en consideración las repercusiones económicas y políticas y por otro las sociales y laborales

ya que es araba en el caso de la comunidad autonoma del país vasco donde más empleo y capacidad económica se destruye el desmantelamiento de foronda no va a ayudar en nada ni a los y las trabajadoras de foronda ni a los y las trabajadoras de jundiz

el cierre de la actividad económica de foronda para las arcas públicas de araba las cuales se encuentran en una situación de emergencia y es que

por otra parte no debemos obviar las consecuencias que tuvo otra gran decisión para el futuro económico de araba

a pancorbo esa decisión fue el principio del fin de foronda y de la capacidad logística de araba esa decisión no fue tomada por el partido popular sino que fue el partido

los que tomaron la decisión en base a intereses que no correspondían con una visión global del país sino de unos intereses muy concretos y muy localizados

horiek guztiak aztertu beharko dira pero lo que está claro es que no podemos de ninguna de las maneras dejar morir el único aeropuerto logístico con el que contamos y menos

sin capacidad de trabajo y sin posible que ese aeropuerto tenga viabilidad

los trescientos sesenta y cinco días del año el aeropuerto de foronda pierde su sentido y sin el puesto de inspección fronteriza el aeropuerto queda herido de muerte en el medio plazo

infraestructuras podremos dar coherencia a los recursos con los que contamos como país y debemos defender que sea foronda el aeropuerto logístico de euskal herria

hoy deberemos impedir su desaparición y lo debemos hacer de una manera contundente

y es que debe ser el parlamento el lugar donde se debe discutir sobre el modelo

y no compartida de política sobre infraestructuras aeroportuarias

es triste ver cómo desde otros grupos hacen ingentes esfuerzos para sacar adelante el macroproyecto fraudulento del tav mientras se renuncia a una infraestructura que ya esta no solo

y que da empleo directo e indirecto a decenas de personas en araba

sí señora presidenta señor barrio

claras algunas cosas en este parlamento la primera por más que utilice los juegos de palabras que ustedes asumen y comparten

y que está llevando precisamente a esta situación de desmantelamiento del aeropuerto de foronda y este es el gran problema por el cual estamos hoy debatiendo aquí y por el cual lo estamos haciendo en todas las instituciones alavesas en las que estamos intentando sacar la cabeza por algún lado

que este aeropuerto siga teniendo vida siga siendo una aportación logística de primera magnitud para el país vasco y por lo tanto siga dando esa oportunidad económica y social que comporta el aeropuerto al conjunto de la actividad socioeconómica del país vasco luego primera aseveración rotunda que queda en esta cámara es que ustedes acompañan al ministerio en todas las decisiones de recorte por más que hagan teatrillo y por más que luego intenten descolgarse con palabras que no van

hoy esta cámara tiene la oportunidad de exigir al ministerio de fomento que unilateralmente no practique un recorte a un servicio que por cierto está resuelto en las competencias que el gobierno de españa da

y en este caso a la comunidad autónoma vasca por la cual recibe también un dinero y que para nada ha sido negociado

recortes de lo que supone el aeropuerto de foronda la segunda cosa que queda clara es que ustedes hoy tienen aquí la oportunidad

hacer lo que vamos a hacer el resto de grupos de la cámara más allá de algunas diferencias o matices que puedan y es que queremos recuperar que el aeropuerto de foronda tenga veinticuatro horas al día de funcionamiento por los trescientos sesenta y cinco días y que atienda aquellas necesidades que se le planteen en cualquier momento por esas características

y competitivas que tiene el aeropuerto de foronda y para esto hay una propuesta política muy clara en la que coincidimos en lo sustancial en lo fundamental todos los grupos políticos de esta cámara y en las que ustedes se van a quedar absolutamente puede ser que el partido socialista haya hecho muchas cosas mal porque desde luego ustedes solo justifican su existencia en la vida su existencia en la política y su existencia en las instituciones por el pasado del partido socialista

ni presente ni futuro y por lo tanto sin el partido socialista serían menos que nada pero por encima de esos argumentos políticos o en fin ni tan siquiera políticos simplemente

hoy aquí se puede hacer una defensa de ese aeropuerto una defensa de su plantilla una defensa de este servicio logístico y ustedes son los únicos que van a estar en contra aquí hay una pluralidad política extraordinaria en este parlamento

todos vemos lo mismo pero ustedes invocando al santo partido socialista resulta que se quedan solos en defensa del desmantelamiento del aeropuerto de foronda no sé cuanto nos habremos equivocado pero desde luego

es que aquí hoy en este pluralismo político en la defensa de este aeropuerto de foronda ustedes no están porque ustedes están con los recortes

y que le pueden echar la culpa al empedrado pero que los han hecho ustedes bajo su responsabilidad y que tienen que responder ustedes porque no pueden ser irresponsables

y la tercera cosa que queda clara en esta cámara es que al alcalde de vitoria que justificó su presencia en este parlamento

en dos instituciones tan importantes solo porque sería

a capa y espada los intereses de vitoria el aeropuerto de foronda le importa un bledo le importa un bledo y por eso no está aquí no le interesa el debate

y de esto tendrán que tomar buena nota todos los vitorianos y vitorianas porque esto es un fraude político muchas gracias eskerrik asko

gracias señora presidenta señor prieto

su bolígrafo no sé si no es suyo pero me lo regala

mire señor prieto ha salido en este segundo turno

lo que queda claro es cuáles son sus intereses en este tema sus intereses no es hablar de su gran fracaso que es aena es hablar del partido popular

metiéndonos puyas o seguir haciendo política de oposición desde aquí al partido popular

lo que asumimos es nuestro compromiso con foronda y con su futuro y en la exigencia de

viabilidad nosotros lo hemos puesto en nuestra enmienda de totalidad nosotros lo trabajamos

autoridades que pueden tener voz en esta materia así lo hacen y así lo están trabajando y en eso se están concentrando usted sí que no ha hecho absolutamente nada por foronda nada

nada por el aeropuerto de foronda y la enmienda y la partida a la que se refiere el señor aldaiturriaga es una enmienda del partido popular para via lo único que ha hecho el gobierno lópez por foronda es decir

del partido popular en una enmienda a los presupuestos ustedes no han hecho nada

se atreven a dar lecciones en este momento en relación con esta cuestión y desde luego nosotros

justifica su existencia en la política para arreglar los desaguisados del partido socialista en toda españa tenemos que

pero para arreglar las cosas que va haciendo mal continuadamente el partido socialista hallá donde gobierna y mire señor prieto el alcalde de vitoria ha hecho

usted lo sabe bien mire señor aldaiturriaga yo tengo que decirle que el partido nacionalista vasco

cuando ha estado en el gobierno vasco en las instituciones forales

nunca ha apostado de verdad por foronda se ha concentrado en otras infraestructuras y miren que han tenido ustedes buenas oportunidades gestionando fondos públicos y fíjese usted incluso en esos presupuestos generales del estado que ustedes acordaban tan amigablemente con el señor

nunca ustedes se han acordado de epsilon

y han metido partidas para epsilon fíjese usted cómo está epsilon ahora fíjese usted ustedes sí que se han acordado de epsilon incluso de algún club de fútbol se han acordado ustedes de en los presupuestos generales del estado pero mire no se han acordado de foronda se han acordado del futuro de foronda de su desarrollo como infraestructura vasca de eso

nunca han creído en foronda ustedes y el partido nacionalista vasco

que foronda merecía la pena y desde luego pues igual ahora tampoco se cree que arasur merece la pena y también apuesta

el gobierno vasco próximamente porque tenemos realizada alguna pregunta pero lo que sí que tengo que decir es que en relación con álava el partido nacionalista vasco nunca ha apostado por foronda esta es una enmienda transaccional la que se nos pone hoy a votación

que no han creído nunca en foronda que nunca han hecho nada por foronda

la diputación de álava el ayuntamiento de vitoria pero estos partidos políticos en sus responsabilidades nunca han hecho anda por foronda y además

algunos de ellos aena como el partido socialista obrero español no han puesto en marcha ninguno de los dos partidos el comité de rutas en relación con la dirección de los aeropuertos y los destinos y una organización de la cuestión sí no se ría señor lópez porque usted tiene mucha responsabilidad en todo esto

yo estoy diciendo la verdad señor lópez de munain berbotsa por favor por favor

pero ante la provocación del señor barrio me veo obligado a ello y tengo que decirle que

no venga aquí disfrazado de lo que no es no quieran presentarse ustedes como los paladines de la defensa del aeropuerto de foronda

el partido por usted representado junto con otros es el responsable de la actual situación de foronda

en los últimos treinta años como le digo y nos culpabilice a los demás de decisiones que corresponden a ustedes

pero es que además señor barrio no es que la situación sea mala que lo es es que todavía puede ser empeorada limitar el horario

el puesto de inspección fronteriza no es la mejor forma de propiciar actividades económicas

en un aeropuerto que funciona solo doce horas y que no posee puesto de inspección fronteriza en fín señoría yo creo que como digo

y lo segundo decirles que vamos a apoyar la enmienda transaccionada

las exigencias van a ser la lucha por los y las trabajadoras de foronda

y sobre todo con una máxima que el ere que hoy por hoy tienen sobre sus cabezas se suspenda

máxima que vamos a poner a la aceptación de esta enmienda transaccionada va a ser que empiece desde ya la tramitación de la competencia y la exigencia de esa tramitación por parte del estado español

no solo foronda sino que otros comités de empresa de toda euskal herria han convocado manifestaciones en bilbo

es dar otra muestra de solidaridad y ahí también se aportan soluciones eskerrik asko

basagoiti jauna el gobierno durante esta legislatura que usted preside

sí ya se ha expulsado al señor que estaba arriba amaitu da eztabaida eta

por puntos de esta transaccional para poder votar a favor de los dos primeros y de este modo mostrar nuestro apoyo al aeropuerto de foronda y votar en contra de los dos siguientes puntos de esa transaccional que viene a pedir la transferencia aeroportuaria

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok la pasada legislatura se modificó la ley dieciocho barra dos mil ocho de veintitrés de diciembre garantía de ingresos y para la inclusión social a través de esta modificación el gobierno vasco

todas las competencias relacionadas con la tramitación y resolución de las prestaciones económicas de derecho

y las cuestiones relativas a la gestión de los convenios de inclusión todo lo que tiene que ver con la elaboración propuesta negociación suscripción y seguimiento de estos convenios

de estas prestaciones económicas previstas en la legislación vigente y que conforman el sistema de protección para buscar

eficiencia junto a la transferencia de las políticas activas de empleo hay una oportunidad de conectar y vincular las prestaciones económicas

es la empleabilidad no el cobro de la prestación sino que estas personas

estas ayudas pero que salgan del sistema de protección cuanto antes es decir que las personas estén en el sistema y reciban las ayudas sociales durante el tiempo que estrictamente lo necesitan es decir que no se cronifiquen en el sistema de protección con la modificación se introdujeron y se cambiaron

que a juicio del partido popular como ya lo manifestamos en su momento y sobre todo porque algunas de ellas fueran instancias precisamente del partido popular

se modificó la normativa vigente y se perseguía el fin último que nosotros desde luego es el que siempre hemos tenido

así se modificaron los requisitos de acceso a la prestación se cambió el requisito de empadronamiento

y también se modificó todas las cuestiones relativas a las revisiones del cumplimiento de los requisitos no solo al inicio cuando se tiene

sino durante la percepción de estas prestaciones antes de las modificaciones las revisiones se hacían anualmente y con las modificaciones

se introdujeron también modificaciones en relación a la extinción del derecho antes

ya con un empleo se inicia el procedimiento de suspensión de este derecho y finalmente se introdujo una cuestión en la legislación vigente

enmienda concreta del partido popular que tiene que ver con la iniciativa que hoy este grupo ha presentado para debate en esta cámara

con la normativa existente en los países más avanzados de la unión europea y con los sistemas de protección más avanzados en la unión europea la obligatoriedad de que los perceptores de ayudas sociales se mantengan disponibles para la realización de trabajos

extraordinaria para realizar estos trabajos obviamente se establecen excepciones

titulares de estas percepciones que están inválidos

menores de veintitrés años que cursen estudios académicos reglados y también

no se encuentren en situación para realizar estas tareas a las que podrían ser

extraordinaria para nosotros era necesario y lo vuelvo a reiterar en coherencia y en consonancia con la legislación de los países más avanzados

normativas más avanzadas en relación a los sistemas de protección

es necesario que se revierta a la sociedad de alguna forma el esfuerzo que la propia

en la financiación de estas prestaciones no en vano en euskadi

y está aquí el consejero presente que lo sabe muy bien y sobre todo que va a tener que elaborar los presupuestos de su departamento prácticamente la mitad del presupuesto

se destina a sufragar y a financiar estas prestaciones económicas en definitiva señorías se trata de configurar un sistema más justo transparente y solidario y esta iniciativa sí que tengo que decir que no es nueva

concretamente fue registrada el quince de junio de dos mil doce una vez

a las que me he referido anteriormente que se aprobaron en el pleno se ratificaron en el pleno se ratificó

viendo también que el partido socialista que es el que ostentaba responsabilidades de gobierno en la anterior legislatura no desarrolló

la previsión contemplada en la ley en relación a esta cuestión el partido popular ya presentó esta iniciativa en el mes de junio

se tramitó porque se disolvió la cámara y se convocaron elecciones autonómicas entendemos que hubo tiempo para desarrollar esta previsión pero

nuevo gobierno y en marcha la nueva legislatura hemos vuelto a plantear esta iniciativa tengo que decir que finalmente viendo las enmiendas presentadas ha sido posible llegar a un acuerdo entre el partido del gobierno en este momento el partido nacionalista vasco

legislatura pasada con el que se aprobó esta modificacióna instancias como decía de una enmienda del partido popular el partido socialista y

a través de este acuerdo el gobierno vasco en el plazo de seis meses tiene que realizar un estudio en el que se van a identificar los ámbitos de actividad en beneficio de la comunidad en relación a lo señalado en este acuerdo yo creo que es un acuerdo importante que yo quiero resaltar

cuestión y sobre todo me parece importante porque va a permitir ya después

de más de un año de vigencia no de la ley sino de las modificaciones que se hicieron en la ley

va a permitir desarrollar esta previsión

hasta ahora en este sentido tengo que agradecer que el partido en ese momento en el gobierno

de alguna forma dar impulso al cumplimiento de esa previsión y también al partido socialista que entiendo que no podía ser de otra forma porque

y con ellos además se aprobaron estas modificaciones obviamente no va a ser posible el acuerdo con upyd porque plantean completamente lo contrario que se suprima este artículo

explicará las razones por las que plantea lo que plantea la supresión de este artículo pero decirle que va en consonancia con lo que se hace en los países más avanzados

de protección más avanzados de nuestro entorno y como también nosotros aquí tenemos

creemos desde el partido popular que hay que ir en consonancia y coherencia con lo que hacen los países precisamente más avanzados y que más

cuestiones por lo tanto upyd entiendo que votará que no y también otro de los partidos que aunque no tiene enmienda votará que no es el grupo eh bildu porque aunque no tiene enmienda va en coherencia ellos plantearon en una iniciativa concreta que ya hemos debatido en esta cámara esaten nuen bezala ezarri da testu bat eta

epean pues obviamente estaremos atentos a la presentación de este y esperemos que sirva ya de una vez por todas para desarrollar la previsión legal contemplada en la ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social que como decía
lleva ya vigente un año y todavía no sabemos nada al respeto nada más y muchas gracias eskerrik asko garrido andrea

sí gracias presidenta decía la señora garrido que quiere que

países avanzados en materia social lo que es obvio es que el partido popular no es un partido políticamente avanzado en materia de asuntos sociales

es cierto que el partido popular suele traer iniciativas relacionadas con asuntos sociales relacionadas con las ayudas sociales pero

para incrementar esas ayudas sociales para garantizarlas para incrementarlas sino más bien para plantear justo lo contrario siempre que la señora garrido va a hacer una rueda de prensa en la que va a presentar una iniciativa

sabemos que va a proponer una iniciativa para recortar las ayudas sociales o para estigmatizar a los que cobran ayudas sociales o para en este caso buscar un artículo

y decir realmente nada porque es lo que ha planteado hoy en el debate que acabamos de tener únicamente usted insta al gobierno a cumplir

a día de hoy no se cumple ni tampoco ha sido capaz de exponer un argumento suficiente como para que nos ilumine sobre la necesidad que tenemos

una hora de nuestro tiempo en debatir un asunto que no tiene en absoluto la importancia que debería tener los asuntos que se debaten

una iniciativa relacionadas con las ayudas sociales es para criticarlas para reducirlas o para estigmatizar a los que cobran las ayudas sociales esa es la realidad de los hechos y por lo tanto nosotros no vamos a entrar en ese juego

de esa enmienda transaccional que ustedes han podido acordar supongo que con dos partidos políticos que intuyo

han tenido que firmar esa transaccional porque así lo dice la ley pero que desde luego seguro que no se sienten cómodos con su habitual discurso lo cierto señora garrido es que en euskadi tenemos más de ciento cincuenta mil desempleados

un empleo y ustedes pretenden que los que perciben ayudas sociales hagan trabajos en beneficio de la comunidad qué trabajos en concreto cuidar ancianos

alfabetizar extranjeros a acompañar a enfermos no parece que sea esto lo que se pretende si leemos bien la ley se dice que se mantenga tanto la

disponibles para la realización de trabajos en beneficio de la comunidad

requeridos por la administración por lo tanto qué entendemos por requerirles de forma extraordinaria

qué momento excepcional cuándo haya unas inundaciones catastróficas como las de mil novecientos ochenta y tres un terremoto una ola de incendios forestales en qué

como ser voluntarios en grandes eventos deportivos como el mundial de fútbol o extraordinario es sinónimo de solo de vez en cuando cuando a la administración le venga bien sin saberse de antemano para qué se precisa esa

llamarlo y en todo caso insisto instar al gobierno vasco a cumplir este artículo de esta ley tiene la suficiente trascendencia como para traerlo a un pleno nosotros pensamos que no creo que la mayoría de grupos piensa que no por cierto señora garrido el sistema de protección social avanzado que existe en euskadi

objetivo no solamente uno no tiene solo el objetivo de efectivamente ayudar a la empleabilidad tiene también otro objetivo que es facilitar una vida digna a miles de beneficiarios este segundo objetivo también lo tiene el sistema de protección social no solo es que estén en menos tiempo posible porque han encontrado un trabajo efectivamente

que mientras no encuentren ese trabajo porque señora garrido no hay trabajo no hay trabajo y que mientras no encuentren ese trabajo que desean encontrarlo pues lógicamente puedan tener una vida digna

esas ayudas sociales lo cierto es que le voy a recordar varios casos en los que se preveía o se prevén trabajos en beneficio de la comunidad y cuyo resultado ha sido siempre

social sustitutoria miles y miles de personas no hicieron la mili al objetar pero es que tampoco hicieron la prestación porque no había sitio donde hacerla

por otro lado están los cambios introducidos en el código penal de mil novecientos noventa y cinco donde por primera vez se recogían expresamente los trabajos en beneficio de la comunidad

en delitos leves o de las multas se definía como una cooperación personal no retribuida en tareas de utilidad pública interés social y valor educativo

tiene que tener consentimiento del penado ser gratuitas y no suponer competencia con el mercado laboral pues bien segundo evidente porque efectivamente no se hace la única excepción es la de los condenados por delitos viales ya que el código penal ha incluido los cursillos de reeducación vial

creo que esto no nos sirve para lo que estamos hablando en conclusión usted ha acertado señora garrido además ha visto nuestra enmienda de totalidad vamos a defender nuestra enmienda de totalidad

para estigmatizar a los beneficiarios de las ayudas sociales ni tampoco es conveniente que se pongan en valor precisamente los artículos peores de determinadas

mayor garantía de cobro de las ayudas sociales propónganos hagan enmiendas para incrementar estas ayudas sociales planteen enmiendas en positivo pero no traigan continuamente a esta cámara debates que sirven para estigmatizar

ayudas sociales en fin tampoco tenemos claro qué es lo que le preocupa a la señora garrido si que ocurra una hecatombe y no podamos ponernos a salvo o imaginar que haya quien pueda estar cobrando las ayudas porque las necesita me parece que más bien le preocupa lo segundo por lo tanto

de esta transaccional que ustedes han firmado gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen

señorías egun on denoi intervengo en este parlamento en representación del grupo socialista con el fin de debatir la proposición de ley presentada por el grupo popular relativa a los trabajos en beneficio de la comunidad de los perceptores de ayudas sociales en la exposición de motivos el grupo popular apela al contenido del artículo

de ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social y en base a ello insta al gobierno vasco a promover los acuerdos y realizar las actuaciones necesarias para que sea real y efectiva la previsión recogida en dicho artículo de la ley quiero resaltar en primer lugar que el objeto fundamental de la ley dieciocho barra dos mil ocho y de la modificación de la misma recogida en la ley cuatro barra dos mil once

en base a ello este parlamento se debe ratificar en la conveniencia de enmarcar el sistema vasco de garantía de ingresos e inclusión social dentro de una estrategia

activa uniendo a las medidas relativas a la garantía de ingresos y la inclusión social las medidas orientadas a la inclusión laboral efectiva con esta reforma hicimos un acto de responsabilidad con ello no solamente apostábamos por un cambio de modelo asistencial

decirle a la sociedad que sobre algunos derechos que hay que sostener solidariamente con el esfuerzo de toda la ciudadanía hay que establecer también algunos requisitos es por ello que el grupo socialista considera que hay que mantener el artículo diecinueve de la ley cuatro barra dos mil once de veinticuatro de noviembre

como los miembros de la unidad de convivencia que se encuentran

para la realización de trabajos en beneficio de la comunidad cuando de forma extraordinaria y repito de forma extraordinaria sea requerido por la administración a través de organizaciones de acción voluntaria del territorio con las salvedades previstas en el indicado artículo

no compartimos la enmienda de totalidad presentada por upyd donde insta al gobierno vasco a iniciar el proceso de modificación

diecinuevei bis en segundo lugar no puedo ni debo pasar por alto las palabras de la señora garrido en varias ocasiones en este parlamento en alusión al hecho de que en europa los perceptores de prestaciones sociales realizan trabajos en beneficio de la comunidad diversos no solo en casos de emergencia

es cierto señora garrido en el caso concreto de alemania todos los parados que están recibiendo la prestación están obligados a aceptar trabajos puntuales para la administración que se pagan a un euro por hora más gastos de transporte como puede ser la retirada de nieve

sustituciones o trabajos de apoyos en guarderías o residencias de la tercera edad públicas monitores de las escuelas de circulación vial para niños etcétera y decir además que en estos casos siguen recibiendo al mismo tiempo su prestación

pierden el derecho a ella pero es importante matizar que este no es el espíritu que recoge el artículo

la nueva reforma laboral aprobada por el gobierno de españa en febrero de dos mil once

contempla este punto pero son las comunidades autónomas las que deciden aplicar la medida quiero dejar claro que no toca debatir si sería conveniente o no ampliar los supuestos contemplados en el artículo diecinueve letra i bis

de la comunidad como ha planteado el grupo parlamentario popular vasco en varias ocasiones los socialistas entendemos que es perfectamente correcto plantear que se pueda movilizar a los perceptores de la renta de garantía de ingresos para que solidariamente ayuden en contraprestación a la sociedad

en esa contingencia social en caso de emergencia pero sin que eso suponga un retroceso en sus requisitos sin que esas labores

la sustitución de puestos de trabajo sin que esos trabajos en beneficio de la comunidad puedan producir un efecto de sustitución que lleve a las administraciones a despedir a trabajadores

para que quienes cobran prestación realicen su trabajo esto afectaría especialmente a las mujeres y no puedo pasar por alto esta cuestión teniendo tan cerca la celebración del día internacional de la mujer que un año más estará marcado por la crisis

que se ceba especialmente con ellas los socialistas vascos defendemos la corresponsabilidad pero también los derechos laborales y debemos ajustar muy bien los dos principios debemos dirigir nuestros esfuerzos a fomentar la protección social a evitar la exclusión social

al mercado laboral los socialistas tenemos claro que no se debe estigmatizar a los perceptores de ayudas sociales especialmente en un momento en el que

el colectivo en riesgo de exclusión social finalmente para terminar decir que hemos firmado una enmienda de transacción con el grupo nacionalista y con el grupo popular

insta al gobierno vasco a realizar en seis meses un estudio que permita identificar ámbitos de actividad en beneficio de la comunidad para la puesta en marcha del artículo

el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que el citado estudio tenga en cuenta que las actividades en beneficio de la comunidad que se identifiquen no puedan ir en detrimento del empleo remunerado

recoge que una vez realizado dicho estudio se presente ante la comisión de empleo políticas sociales y vivienda besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

implica un mínimo de rigor por parte de los diferentes grupos representados en esta cámara no se pueden modificar y volver a modificar las leyes dependiendo del color del partido que se encuentre en el gobierno máxime

el artículo diecinueve punto unoi bis establece tal y como se ha dicho una nueva obligación y leo literalmente

disponibles para la realización de trabajos en beneficio de la comunidad cuando de forma

sea requerido por la administración a través de acción voluntaria del territorio y continúa el artículo estableciendo salvedades a dicha obligación que ya han sido explicadas por la señora garrido

habla de la necesidad de estar disponible para realización de trabajos en beneficio de la comunidad de forma extraordinaria quiero recalcar este de forma extraordinaria

defendemos la ley en vigor y compartimos la necesidad de desarrollar la norma para su efectivo cumplimiento pero con límites claros uno

porque el propio tenor literal del artículo dice que será de forma extraordinaria por lo tanto creemos imprescindible la realización del estudio identificando dichos ámbitos

algo extraordinario en algo normal o usual y segundo además entendemos que estos trabajos realizados a favor de la comunidad en ningún caso nunca pueden ir en detrimento del empleo remunerado por lo que insistimos

mucho mejor y creo que el señor maneiro por lo menos con las explicaciones que ha dado aquí

leído este segundo apartado de la enmienda transaccional a la que hemos llegado porque en todo caso décimos que estos trabajos no podrán ir en contra

no de contraprestación y lo queremos dejar claro no de contraprestación se debe buscar la inserción social plena

la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda o insuficientes un medio y acicate para ello para esa inclusión

y menos de ayudas sociales la creación de una prestación social sustitutiva servicios a la comunidad se dice para la obtención de un derecho implica la comparación efectiva entre una persona perceptora de un derecho social con quienes son sancionadas

no es de recibo desde nuestro punto de vista sabemos además que un gran número de personas receptoras son mujeres y nos preocupa

ematen la propuesta planteada por el grupo popular está totalmente fuera de lugar las personas que están en esa situación de vulnerabilidad que han perdido el empleo que cada vez son más personas porque no hay empleo no se merecen ese trato

deuda por no tener los recursos necesarios para poder vivir con dignidad se les controla un control en muchos casos fuera de lugar tuve ocasión de decirlo

unas sesiones atrás cada vez tienen condiciones

y además ahora se les va a pedir una contraprestación todo eso por no tener empleo entre otras cosas empleo que no existe alderdi sozialistak ez dut

sí gracias señora presidenta bueno lo ha dicho muy claro ahora la portavoz de eh bildu pero señor maneiro y señora de eh bildu

y veintidós en contra eh bildu y upyd pues una mayoría de esta cámara

esta previsión y es que es algo de justicia va en coherencia como he dicho con las normativas más avanzadas de los países europeos va en coherencia con lo que se ha hecho en alemania que la señora sarasua lo ha explicado muy bien

en esta cámara en numerosas ocasiones con lo que se hace en los países

justo y solidario con la sociedad que aquellos en los que la sociedad está haciendo un esfuerzo también absolutamente justo solidario para que aquellas personas que no tienen recursos suficientes que están en situaciones de necesidad

sus necesidades es absolutamente lógico y de justicia

ese esfuerzo que se hace que precisamente en el país vasco es ocho veces más que en el resto de españa y que

lleguen a los que realmente las necesitan y los que tienen que estar en el sistema están

la hemeroteca correspondiente le voy a recordar que este grupo a través de numerosas enmiendas a los presupuestos de estos señores de los señores del partido nacionalista cuando además gobernaban con ea y con izquierda unida ezker batua presentaban enmiendas a todos los presupuestos para que precisamente estas partidas fueran ampliables con ese objetivo con que las ayudas lleguen realmente aquellas personas que los necesitan pero aquellas personas que no tienen que estar en el sistema

a los que realmente la necesitan y ahí están instituciones

pues que se ha puesto las pilas en esta cuestión y lo tiene muy claro las ayudas sí pero para aquellos que realmente lo necesitan y por el tiempo que lo necesitan porque el objetivo final es que estas personas entren

oportunidades y no se cronifiquen en esas situaciones por lo menos esa es la política del partido popular

precisamente el ayuntamiento de vitoria con los controles que se han puesto en marcha con las competencias que tiene la institución

irregular personas a las que se les llamaba y en muchos casos

entonces señor maneiro vamos a ver si estamos apegados a la realidad porque me da la sensación que no está ni apegado a la realidad que bueno que también me parece que citar aquí el número de parados y no saber exactamente el número de parados que tenemos no son ciento cincuenta mil son ciento setenta y cinco mil doscientos ochenta y dos mil o sea que usted quiere hacer tanto bueno pues referirse tanto a la realidad y que está

adecuadamente el número de parados que tenemos en esta comunidad o actualice

es un drama y precisamente lo que está haciendo el partido popular es intentar

para que estas personas tengan oportunidades

la legislación vigente desarrollar una previsión legal porque simplemente es una cuestión de justicia

en las normativas europeas en los sistemas más avanzados

con pedir una contraprestación esto es simplemente que cuando haya una nevada

estamos haciendo un esfuerzo importante desde todos los dispositivos que se ponen en marcha por los ayuntamientos por las diferentes instituciones que se coordinan ayuntamiento diputación

todo el mundo que tiene un comercio pues que también estas personas que reciben una ayuda

por ejemplo colaborar en una situación de emergencia como puede ser una nevada

que no fue acorde a las previsiones que se dijeron por lo tanto hay mucho que hacer y va en coherencia maneiro y señores de eh bildu según con lo que se hace en los

se fijan en los países más avanzados pues miren esto es lo que hacen los países más avanzados eskerrik asko garrido andrea mistoa

gracias señora presidenta señora garrido el noventa por ciento de su discurso lo ha dedicado

a hablar de fraude a plantear sospechas a hablar de abusos a hablar de controles el noventa por ciento de su discurso otra vez en esta cámara se ha ceñido

pesado usted otra vez

rancio y reaccionario del partido popular en lo que se refiere a las ayudas sociales otra vez los mismos asuntos estigmatizar a los beneficiarios hablar de fraude y hablar de que las ayudas no llegan a los beneficiarios esto es

lo único novedoso del debate de hoy es que efectivamente está presente el señor maroto es lo único novedoso del debate porque habitualmente efectivamente no suele estar y parece ser que este asunto

es importante para él pues bien hay otros asuntos mucho más importantes que este apenas se ha dedicado un minuto para argumentar la aplicabilidad de este artículo ha hablado de todo los demás por lo tanto no compartimos ese artículo

y tampoco compartimos su discurso rancio y reaccionario por lo tanto

nuestros argumentos efectivamente usted ha podido comprobar que tanto la representante del grupo nacionalistas vascos como la representante del grupo socialistas e incluso le han vuelto a criticar a usted por hacer otra vez este discurso

el grupo socialista porque es una ley suya donde se incluía efectivamente este artículo y el grupo nacionalista porque no plantea modificar esta ley pero lo cierto señora garrido hablando de mayorías y de minorías es que en esta cámara

hay una mayoría inmensa de parlamentarios que no su discurso habitual de pretender estigmatizar a los beneficiarios de las ayudas sociales esa es la realidad si quiere usted hablar de mayorías y de minorías

a este parlamento este debate le dicen claramente que usted no tiene razón y que se dedique por favor a otro tipo de cuestiones plantee mejoras en las ayudas sociales

bajo sospecha a los beneficiarios de las ayudas sociales por lo tanto efectivamente votaremos en contra de esa transaccional muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna

al señor maneiro que diga que hemos defendido esta propuesta como buenamente no la hemos defendido como creemos me remito al texto que recoge

claramente que tanto la persona titular de la rgi como los miembros de la unidad de convivencia

para la realización de trabajos en beneficio de la comunidad cuando de forma extraordinaria y me repito de forma extraordinaria sea requerido por la administración

de acción voluntaria del territorio con las salvedades efectivamente que recoge en el propio artículo

no tiene la obligación de participar en labores de utilidad social no se trataría de llamar a los perceptores o preceptoras de la rgi

equipos de limpieza y reparación de un monte tras un incendio forestal y mucho menos formar parte de un retén de bomberos para luchar contra el fuego

extraordinario en este artículo y unas determinadas condiciones

además se deberá de tener en cuenta que la persona requerida debe de tener actitudes físicas y profesionales para llevar

requerida y que esta debiera de desarrollarse en un ámbito relativamente cercano a la localidad efectivamente la representante de eh bildu al colectivo de mujeres y entendemos que todas las cuestiones que en torno a este colectivo hay que tener en cuenta como la conciliación de la vida familiar

también el concepto de poder tenerlas en cuenta en este tipo de servicios extraordinarios y sobre todo lo que he dicho en mi anterior

sería en detrimento del empleo y de los trabajos remunerados por lo tanto la posición del partido socialista la defendemos porque es la que creemos

como usted bien ha dicho de la renta de garantía de ingresos no se deben de estigmatizar y ellos mismos estarían muy gustosos de colaborar en aquello que es bueno para la sociedad vasca

nunca podrán ser realizados estos trabajos a favor de la comunidad en contra del trabajo remunerado por lo tanto

de ayudas sociales estamos de acuerdo con la representante de eh bildu con la señora

habrá que hablar de eskubide sozialak de derechos sociales le recuerdo como ya le recordé en un pleno anterior que esa ley en la cual

fue aprobada con amplia mayoría en este parlamento pero con el voto en contra

esfuerzo de la sociedad berriro ere susmopean

invierte ocho veces más que en el estado baina hori ona izango dela

ya colaboran con la sociedad los parados y las paradas las personas que están en riesgo

o en la pobreza colaboran con la sociedad denunciando su situación la situación en la que viven movilizándose en defensa de un estatus de vida digno y haciendo propuestas para poder trabajar a favor de una sociedad más justa eso también es colaborar para la sociedad lehen esan duda bezala ere berriro esango dut

komunitatearen aldeko prestazioa entzuten dugunean la prestación social sustitutiva

ampliamente consensuada en la cámara con el otro grupo enmendante porque

tuvimos ocasión de constituir una ponencia para estudiar la posibilidad de la actualización del derecho civil foral vasco y trabajos en ponencia que se desarrollaron a lo largo de la octavo legislatura lo que queda claro es la necesidad por el tráfico mercantil y jurídico

tuvo sus limitaciones a la hora de la actualización era la primera que se hacía y había cierta reticencias en ámbitos académicos y

diferentes ámbitos manejan algunos borradores de proyectos de ley de modificación del derecho civil y es por lo que pasada la legislatura pasada en la cual tuve diferentes contactos como responsable desde el gobierno de esta competencia de actualización del derecho civil con los actores

en euskadi que trabajan en esta área fundamentalmente con la academia vasca del derecho

de abogados con el departamento de derecho civil de la universidad del país vasco para tratar de consensuar entre toda la comunidad del derecho civil foral una propuesta que se pudiera traer a la cámara para su aprobación no fue posible en la legislatura

es por lo que en esta legislatura presento esta iniciativa de constitución de una comisión para que en ella comparezcan expertos

comparezcan demasiados pero sí los principales expertos y que podamos llegar a consensuar un texto de reforma del derecho civil vasco y que en esta legislatura

esa reforma esa actualización que todos creemos necesaria y que yo creo que ha llegado el momento

ha estado en debates anteriores conoce el tema perfectamente y aquí lo interesante es arrancar el trabajo en ponencia conseguir un texto articulado consensuado entre todos

al pleno de esta cámara para su aprobación y así conseguir que los ciudadanos vascos tengamos una única vecindad civil

a la hora por ejemplo de hacer testamento nada más y muchas gracias eskerrik asko mendia andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandan euzko abertsalearen

para decir que estábamos a favor de la iniciativa original de la transacción

una serie de cosas sí queremos dejar clara también alguna es decir

desfiló todo el mundo por esa ponencia y por lo tanto digamos que no hace falta volver a recibir o a que desfile

que se va a crear yo solo quiero recordar a la cámara que estamos hablando de derecho civil que se basa en la libertad de los individuos y que por lo tanto

desde que se aprobó la última ley o la anterior porque el derecho civil en fin normas tenemos con más de cien años que nadie se plantea que hay que modificar

y por lo tanto no es una cuestión de tiempo sino que es una cuestión de resolver problemas a los ciudadanos que evidentemente puntuales con el paso del tiempo se pueden producir yo

un pequeño matiz que supongo que en esto de como hay que hilar dos textos que son casi iguales pues hay que poner aquí una palabra

evidentemente el procedimiento no puede ser reglamentario debe ser legal porque estamos hablando de una ley de la modificación de una ley y por recordarle a la señora otadui la iniciativa legislativa es del parlamento sí

sí y en este caso siempre ha sido de las juntas generales de cada territorio y digo por recordar que cada uno de los libros en que se componía la actual ley

y también por recordar en fin cuando alguno planteamos hacer alguna enmienda para mejorar algo se nos dijo mejor no hacer que viene como viene por lo tanto la iniciativa legislativa

la verdad es que no esperaba tener que recoger este segundo turno de palabra pero usted parece que se lleva la palma en buscar desacuerdos donde había o debería haber

verdaderamente a lo mejor va a resultar difícil que se apruebe un derecho civil vasco en esta cámara si finalmente su posición va a ser la que parece que es aquí no se trata evidentemente de ponerse medallas nadie se ha intentado poner medallas por eso precisamente no lo incluí en el calendario legislativo a pesar de ser competencia de mi departamento

en el campo del derecho civil a las diputaciones que son quienes tienen las competencias y por la búsqueda de un consenso amplio lo que me dediqué es a hablar con ellos y a trabajar en silencio y acudir de vez en cuando a alguna charla

y en este mismo momento cuando le pasaron a usted este asunto para llevarlo en el pleno

si queremos tener una única vecindad civil y darle utilidad al derecho civil foral que bastante exiguo es y además bastante poco se usa en el tráfico habitual

y de trabajar más por el bien común pero si esta va a ser la actitud del grupo nacionalistas vascos como ha dicho el señor de eh bildu hay otros proyectos encima de la mesa como es el de la universidad del país vasco

zurea da hitza sí gracias presidenta voy a ser muy breve hay un acuerdo
transaccional que hemos firmado con todos los grupos enmendantes por lo tanto en primer lugar agradecer al resto de grupos

por las enmiendas presentadas la mayoría de las cuales o todas ellas en definitiva bueno pues estaban bien y eran todas ellas aceptables agradecimiento al resto de grupos no me da la sensación de que este sea un asunto menor aunque el debate no vaya a extenderse demasiado porque hay un acuerdo creo que no es un asunto menor y en todo caso nosotros estaremos vigilantes para que efectivamente lo que aquí se ha pactado y a lo que se le insta al gobierno vasco pueda cumplirse por lo tanto lo que dice la enmienda transaccional es lo siguiente el parlamento

a que con respeto a la legalidad vigente y en aras a conseguir la máxima transparencia amplié y mejore la información económica y societaria relevante determinada de una forma

histórica de las entidades que componen su sector público así como de las entidades participadas a las que se refiere la ley seis barra dos mil doce de uno de marzo por la que se modifica el texto refundido de la ley de principios ordenadores de la hacienda general del país vasco la ley de control económico y contabilidad de la comunidad autónoma de euskadi y la ley del tribunal vasco de cuentas públicas

mayoritariamente por el sector público de la comunidad autónoma de euskadi y que mediante su difusión en lugar destacado en la web institucional del gobierno vasco puedan ser de público conocimiento por lo tanto se trata de garantizar

de salvaguardar el derecho que tienen que tenemos todos los ciudadanos a acceder a la máxima información posible sobre el destino y el uso

y asegurar la máxima transparencia posible de modo que se puedan romper las barreras actualmente existentes entre lo que viene a denominarse la gestión de la cosa pública y el conjunto de los ciudadanos por lo tanto es una iniciativa en aras

de la opacidad el objetivo es que cualquier ciudadano a través de la web del gobierno vasco pueda acceder a los datos relevantes de todas estas empresas públicas semipúblicas entes fundaciones etcétera ese es el objetivo por lo tanto

semejante la presentamos durante la pasada legislatura tuvimos éxito lo cierto es que ahora hemos logrado un acuerdo mucho mejor y lo que debo decir es que obviamente estaremos vigilantes para que esto que hoy pedimos al gobierno vasco pueda llevarse a efecto cuanto antes nada más y gracias

gracias señora presidenta intervengo en nombre del grupo popular para manifestar nuestra postura en relación con la iniciativa presentada por el grupo upyd

de otra que ya se debatió en la legislatura anterior y

a los que contiene la enmienda de totalidad que ha presentado el grupo popular

la iniciativa tal y como la enumeraba y con los datos que solicitaba no la veíamos procedente por cuanto

ya se estaban publicando y en otros se podría vulnerar la legislación no obstante sí que creemos que es un tema

que el tema de la transparencia de las instituciones es fundamental y esto ha sido algo que el partido popular ha defendido en esta cámara

que esta iniciativa que el señor maneiro ha planteado en varias ocasiones ha sido una reivindicación del partido popular manifestada una y otra vez en controles al gobierno a los sucesivos gobiernos nacionalistas y tenemos que decir que la legislatura anterior probablemente con sus más y con sus menos marcó un antes y un después en este tema y me voy a explicar por qué

ha estado reivindicando y pidiendo y solicitando a los diferentes gobiernos nacionalistas

sobre el entramado institucional éramos conscientes de que había un gran contingente de gasto en sociedades públicas

que no éramos capaces de controlar desde el parlamento porque estaban absolutamente opacas en numerosas ocasiones se solicitaba a los diferentes consejeros

y era algo que desde el partido nacionalista vasco no se veía oportuno tenemos que decir que hasta tal punto el partido popular considera y sigue considerando que es importante conocer y tener estos datos y que además sean públicos y que los ciudadanos los puedan conocer que la exigencia

fue uno de los puntos que formó parte del acuerdo de bases con el partido socialista de euskadi

realmente en este aspecto con sus más con sus menos probablemente si nos pusiéramos a analizar

consideraríamos que no fue así pero si que es verdad

en la página web del gobierno vasco todos esos datos que hasta entonces era una auténtica maraña y era una auténtica opacidad respecto a cuál era realmente el número y el volumen de esas sociedades públicas su composición a qué se dedicaban y mucho más

que el hecho de que en esta legislatura también el gobierno del partido nacionalista vasco el grupo nacionalista vasco firme

de plantearse la posibilidad de que no solo estas iniciativas

de determinados grupos parlamentarios sino que sean modificaciones legales legislativas obliguen de una forma natural a que los gobiernos sean transparentes y muy especialmente este gobierno vasco por tanto simplemente felicitarnos del acuerdo al que hemos llegado

creo que es un buen acuerdo pero sobre todo lo que vamos a ser es exigentes en cuanto a su cumplimiento

que me alegro además de que el partido nacionalista vasco establezca como una prioridad esa transparencia que repito

mucho tiempo pues no la consideraban como tal muchísimas gracias eskerrik asko quiroga andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkari den carro jaunak dauka hitza

en este debate de dos mil once explicábamos cómo la página web de economía y hacienda se puede acceder a la información pública sobre cada entidad y sociedad

a cabo por el tribunal vasco de cuentas públicas como es de sobra conocido

hablábamos también de como el departamento de economía y hacienda debe elaborar el plan de auditorias cada año

además de la inspección financiera habitual el departamento de economía ordenó que esas empresas inspectoras elaborasen dos informes más un informe relativo al cumplimiento de la legalidad

decíamos también este debate que se estaba tramitando la ley seis barra dos mil doce una ley que aprobábamos por una unanimidad y que complementa el control de entidades participadas

decíamos también que la información estaba ya publicada en la web a falta de las recogidas

de estas entidades financiadas y participadas mayoritariamente por este sector público porque hoy en día señorías lo que es la transparencia y la publicidad de los datos de estas sociedades quiere decir en este siglo veintiuno que

porque es aquí donde podemos discrepar de si la información está accesible o no

de que esta accesibilidad de la información ya depende más de en cuál de las dos categorías estemos ya clasificados pero como individuos

hay dos categorías una que son los inmigrantes digitales que son los que tenemos más de treinta años en este dos mil trece y por tanto la información siempre nos cuesta más localizarla y los nativos digitales por tener menos de treinta años en este dos mil trece y la información ya no les cuesta nada localizarla y la buscan más intuitivamente que nosotros

hemos solicitado en esta enmienda de transacción colocar esta información destacada

es cierto lo que nos comentaba la señora arantza quiroga de que tuvo un pequeño altercado con el gobierno hace dos legislaturas

pero gracias a este parlamento simplemente con esa notificación

le ocurre como yo que está en esa categoría que no voy a volver otra vez a determinar y efectivamente esa información informática nos cuesta más localizar

en la anterior legislatura este grupo parlamentario también sufrió eso que usted sufrió en esa legislatura y usted fue presidenta

nosotros pudiesemos acceder a esa información con lo cual esto es un proceso

imponiéndole al gobierno lo que tiene y no tiene que traer eskerrik asko eskerrik asko carro jauna euskal sozialistak taldearen

una enmienda transaccional en la que se trata de

que haga un histórico para que así también se puedan hacer comparativas y establecer conclusiones de todas las sociedades públicas todo el sector público vasco pero también todas aquellas sociedades o entidades participadas por parte del gobierno vasco

debo decir que esta es una tarea que se inicia lentamente y que en la legislatura pasada es cuando coge

es una web institucional donde la información que encuentras es la información real que además se actualiza

al día y donde el gobierno realmente vuelva toda su actividad y toda su documentación y sobre todo también hay que decir

este tema de conocer las entidades participadas todo el sector público es interesante saber en qué se gastan

el perfil del contratante el perfil de las empresas adjudicatarias ayuda mucho a conocer en qué se gasta el dinero del presupuesto para ordenar todo este panorama es verdad que

como la tramitación de las leyes lleva a su tiempo en el seno del gobierno aprobó el consejo de gobierno un acuerdo por el cual creábamos un censo y lo ubicábamos físicamente en la oficina de control económico

reflejadas todas las constituciones de asociaciones sociedades fundaciones etcétera que tuvieran algún tipo de participación de capital público para así facilitar al propio gobierno el control de todos sus departamentos y de todo aquello que podrían crear sus departamentos ya se ha hablado en esta cámara en más de una ocasión de las dificultades con las que se encontró

vicelehendakari del gobierno vasco ante la imposibilidad de dar una respuesta acertada e igual en diferentes ocasiones a esta cámara y nosotros también al inicio de la legislatura en preguntas o solicitudes de información documentada del grupo proponente nos encontramos con una dificultad

por lo tanto hay que clarificar el panorama yo creo que el que aparezca en la web institucional está bien aquí todo el mundo habla de transparencia pero la verdad es que ha habido bastante poca transparencia en las instituciones vascas todavía hay algunas que son bastante opacas y yo quiero decir que la transparencia de verdad y ahí es donde lo hilo con el discurso que ha hecho el representante del partido nacionalista vasco sobre inmigrantes y nativos digitales yo creo que

a cada uno como quiera lo importante es la transparencia en crudo y la posibilidad de dar los datos en crudo para que la ciudadanía

y sacar sus propias conclusiones como por ejemplo recientemente se ha podido hacer en la web de el país con una serie de volcado de documentación que han hecho metías el dato que buscabas ellos cruzaban los datos lo que exactamente buscabas por lo tanto el futuro de la transparencia y el único camino y el verdaderamente importante y el que va a facilitar y ahorrar dinero a las administraciones y a las empresas y a la ciudadanía

que se colgaran en crudo si este gobierno va a seguir con ese proyecto que no lo sé en open data muchas gracias eskerrik asko mendia andrea

guztietan ere la información económica y societaria que se ofrezca debe ser lo más accesible posible para todas las personas respecto a su propuesta inicial todos los puntos que aparecían en el texto original

nos parecen oportunos sin embargo el concretar tanto cada uno de los puntos sobre los que se debería de informar en la página web del gobierno vasco nos parecía que lejos de ofrecer la mayor transparencia posible pues podría encorsetar un poco

talde guztien asmoa por lo tanto nosotras vamos a votar a favor de la proposición no de ley que nos plantean y lo décimos sin ningún tipo de complejo porque a diferencia de usted señor maneiro nosotras siempre votaremos a favor de los contenidos

ciudadanía y repito nos fijaremos en los contenidos y no en el grupo que los presenta

sí gracias presidenta de manera muy breve para decir que

en parte de la señora garrido de lo planteado por la señora garrido y de la señora mendia

optimista de los supuestos avances que se han producido durante el gobierno socialista yo creo que no se han producido

avances quizás es que antes no se había hecho nada sobre la materia y el gobierno socialista algo hizo pero desde luego a nuestro entender más bien se hizo

no pensamos señora mendia que el gobierno anterior actuara a velocidad de crucero eso me parece

exagerado ya digo ni en lo que se refiere a la reducción del entramado empresarial público algo en lo que no se avanzó prácticamente nada ni en lo que se refiere a la transparencia

todas las solicitudes de información documentada que planteamos durante la pasada legislatura

en concreto cuando preguntábamos por el número de entes fundaciones empresas públicas semipúblicas etcétera

gobierno pues nos daban cifras distintas en función

a otros grupos parlamentarios con lo cual no parece efectivamente

que hubiera tanta disposición y tanta transparencia como ahora se pretende decir de hecho

y las deseamos en innumerables ocasiones para poder acceder a información que nosotros considerábamos y consideramos relevante de hecho en un pleno de control usted poco menos que me acusó de paralizar la acción

porque nosotros lo que pedíamos era información acerca de todas estas empresas públicas entes fundaciones concluyo que no parecía que estuviera tan organizada

para desarrollar esta labor en definitiva creo que hay mucho que avanzar hay muchísimo que avanzar se lo debemos a los ciudadanos

hoy hemos firmado es bastante más ambiciosa que la que ustedes firmaron

año y medio y que creo que no tenía otro objetivo que echar para atrás la propuesta original en aquel caso de upyd por lo demás efectivamente upyd seguirá siendo coherente y seguirá defendiendo pues todas aquellas ideas en las que cree y votando por lo tanto en consecuencia

para terminar muchas gracias a todos los grupos que han firmado la transaccional y al conjunto de parlamentarios de esta cámara que votará finalmente a favor de esta iniciativa gracias

gracias presidenta y si me permite desde el escaño realmente no iba a intervenir esta

las palabras del señor carro me han recordado algo que leí hace poco que para ser una persona libre uno tiene que tener un sabio olvidar

y yo había olvidado ese episodio al que usted hacía referencia nada tiene que ver con lo que usted luego ha comentado no era un problema o no de que esta parlamentaria sabía o no buscar la información en la página web sino el gobierno vasco entonces del partido nacionalista vasco lo que nos decía era que la información que yo pedía era tan voluminosa que tenía que ir a lakua a verla y a diferencia de lo que ocurría la legislatura anterior

por esto se daba ese amparo esta parlamentaria nunca recibió el amparo de la mesa cuando la presidencia era del partido nacionalista vasco yo lo había olvidado de mi memoria porque hay cosas que realmente uno tiene que olvidarlas para poder seguir adelante pero es que usted me lo ha recordado y encima me lo ha recordado de una manera

y lo que ocurría era que cada vez que pedíamos información relativa a las sociedades públicas se nos negaba y no podíamos acceder a esa

y que entonces estábamos generando un gasto para el gobierno vasco lo que estamos haciendo ahora precisamente

actuales para poder tener esa información a través de una página web pero no le estoy hablando de hace veinte años le estoy hablando de hace muchos menos años en los que realmente ya existían los correos electrónicos y demás para poder tener acceso a esa información no quería intervenir pero me parece que yo quería dejar esto bien claro

en la transparencia en conseguir esa información que

es un derecho para los parlamentarios pero también para los ciudadanos la página web del gobierno vasco puede ser

eskerrik asko batzordeburua me he debido expresar mal porque yo no quería

sí que reconocía de que a usted le habían negado esa información me recordaba yo

recordaba perfectamente que usted había tenido que ir al gobierno a controlar todo ese

anterior tampoco todavía no había evolucionado en algunos casos sí en otros no pero bueno la información está

pero yo creo que nos podíamos quedar también con esta figura y es vayamos a la prueba del algodón es decir vayamos

pongamos el gobierno de españa usted cree que si yo entro en la página

encuentro su programa legislativo encuentro su programa de gobierno encuentro esas cosas ahí en esa página si analizo

de las fundaciones más transparentes y analizo qué me encuentro el ayuntamiento de bilbao y qué es el ayuntamiento de bilbao un ayuntamiento gobernado mayoritariamente por el partido nacionalista vasco

eso de que creo que la transparencia con el partido nacionalista vasco

bueno parece que hoy es el día que a pesar de que firmemos los acuerdos todos tenemos que intervenir porque suele pasar que nos metemos el dedo en el ojo yo por empezar por el final señor carro

la portavoz del grupo popular nosotros nos encontramos al gobierno vasco en el índice de transparencia en la cola y lo hemos dejado a la cabeza espero que esto

permita que el gobierno vasco siga siendo puntero como es ahora mismo en el seno del conjunto de las comunidades autónomas de españa qué le voy a decir señor maneiro el bosque de treinta años de autogobierno en euskadi es muy grande muy extenso

podemos ser capaces de dar dos y tres respuestas diferentes lo fue también el ejecutivo del señor ibarretxe

y controlar lo que tenía yo creo que aquí se trata de avanzar es decir no solo que los parlamentarios a través de los presupuestos generales de la comunidad autónoma tengamos conocimiento no solo del sector público

de todo el dinero público que sale de la administración vasca hacia otras empresas en las cuales participa o fundaciones yo creo que esa es la senda por la que tenemos que progresar

en la web institucional del gobierno vasco lo que facilita es que el resto de la ciudadanía lo conozca al mismo tiempo que nosotros que somos sus representantes en cuanto a la

me puede perdonar usted pero no puedo dejar de contestarle aquello fue porque una cosa es que el parlamentario

solicite preguntas al gobierno que este pueda responder y otra cosa es que le exija al gobierno que genere documentación que no existe y aquello por voluntad del consejero de economía supuso que una funcionaria de la oficina de control económico estuviese dedicada en cuerpo y alma

folios de preguntas sucesivas y que a mí me ofendió mucho